ezagutza tekniko eta zientifikoaren gunea izango dena una de las principales novedades de este proyecto de ley de conservación del patrimonio natural de euskadi

y existe un consenso internacional sobre que los dos mayores retos a los que se enfrenta la humanidad en estos momentos

nuestro bienestar y el de generaciones futuras dependen de la conservación de ecosistemas sanos que contribuyan a regular inundaciones

y nos protejan de eventos meteorológicos adversos y de futuras pandemias en este sentido la norma que se presenta busca fortalecer la capacidad del patrimonio natural y especialmente de los bosques para absorber ce o dos

esta ley de conservación del patrimonio natural nos ofrece la oportunidad de remar en esa dirección recuperar los bosques los suelos y los humedales

además necesitamos conjugar el binomio conservación del patrimonio natural con el desarrollo económico y social y concretamente en cómo

o el sector agrario además de los beneficios asociados a la salud y al bienestar de las personas legea aurrera aterako da

eta zorionak eman guztiok artean lege hobe bat dugulako voy a citar brevemente los cambios más importantes que se han producido

hacen referencia y con esto daría por finalizada mi intervención en primer lugar en cuanto a la exposición de motivos se ha procedido a redactarla de un modo más ordenado y descriptivo del contenido de lo que va a ser la ley explicando las razones por las cuales es preciso este nuevo marco jurídico de una ley de patrimonio natural en euskadi en cuanto a esa relación patrimonio natural y cambio climático se ha redactado de un modo más preciso el artículo nueve

con el fin de mitigar el cambio climático y conservar el patrimonio natural para adaptarse a dicho cambio

ambiente al consejo se le atribuyen funciones en relación con la conservación del patrimonio natural y destacar entre otros aspectos que se señala informar los instrumentos de planificación y gestión de los espacios protegidos del patrimonio natural durante su fase de elaboración o modificación conforme a prescripciones de esta ley además en materia de patrimonio natural y en cuanto a su planificación los instrumentos de planificación que se contemplan

y procedimiento de aprobación también así como la relación jerárquica que existe entre los instrumentos que se han citado

enmienda de eh bildu se establece que la estrategia vasca de conservación del patrimonio natural

las políticas de las diferentes administraciones públicas con competencia en el territorio autonómico de euskadi en cuanto al régimen de vigilancia de inspección

inspector para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley y se ha reordenado la tipificación de infracciones de modo que evitamos solapamientos que se pudieran producir entre infracciones más graves aquellas que son graves y las leves

la comisión de coordinación en materia de patrimonio natural también se ha simplificado en cuanto a su descripción y las funciones

y se constituye en un órgano consultivo y de cooperación que regulará

interno y a tal fin se señala expresamente que es un órgano consultivo de cooperación técnica entre las administraciones competentes de la comunidad autónoma del país vasco

finalmente recordar que se trata de una ley que consta de ciento nueve establecidos en siete títulos con cinco disposiciones adicionales seis disposiciones transitorias dos disposiciones derogatorias y tres disposiciones finales

mire en primer lugar quiero agradecer al señor la disposición del señor tellería a la hora de admitir y transar nuestras enmiendas que han sido recogidas en su gran mayoría esto viene siendo porque cuando se coincide en la necesidad de refundir un texto

pues al final se consigue una ley con un texto clarificador

de manera más sencilla iniciamos la lectura del proyecto sabiendo que existían unos mínimos que queríamos que esta ley recogiera y así ha sido por lo tanto

que votaremos favorablemente al dictamen salvando una de las enmiendas que para nosotros es importante que era el mantenimiento

de conservación del patrimonio natural en el país vasco en el artículo doce

ley hemos influido en la redacción para la mejora de la comprensión del texto pero también en la mayoría de sus artículos aumentando el nivel de protección de nuestra naturaleza

en fin estamos satisfechos por haber influido en este texto necesario para el cuidado de nuestra naturaleza lo que sí que nos generaba un poquito de dudas era si es importante un régimen sancionador cuando las personas que van a aplicarlo

tengan la formación necesaria para poder llegar a aplicarlo y entender lo que sucede en el medio natural cuando se incumple

uno de los artículos de esta ley y sin embargo también

y es por todos conocido el inconveniente que genera este otro proyecto por lo tanto esperamos que

que aprobaremos hoy de protección del medio natural no quede

seguramente que se está tramitando en estos momentos y que seguramente sea aprobada en breve no quiero aportar nada más porque ya se ha dicho todo en su primera intervención decimos que es una buena ley que conservará el patrimonio natural y que nos ayudará a ser más resilientes frente al cambio climático

bozkaren zergatia azalduko nuke aldi berean estas son algunas de las enmiendas

aceptadas en nuestra enmienda número seis hace referencia a los acuerdos voluntarios y a las declaraciones de utilidad pública

no sabemos realmente porque no se explicita bien en la ley si se va a aplicar la declaración de utilidad pública cada vez

vaya en contra de alcanzar los objetivos de esta ley no se sabe porque lo que hasta ahora se ha hecho es pedir permiso para restaurar y cuando el titular del terreno ha dicho que no

por lo tanto es un instrumento de poca utilidad si nos fijamos en lo que se ha hecho hasta ahora en nuestra enmienda número veinticinco pretendíamos prohibir ciertas instalaciones y actividades en espacios protegidos

veintitrés creemos que es necesario establecer cuanto antes zonas de exclusión o prohibiciones a determinadas actividades económicas cuando se ubiquen en espacios naturales protegidos

como protegida en base a estudios científicos luego se permita tras una declaración de impacto ambiental la instalación de parques eólicos o de un pozo de gas en medio de una zona de un espacio protegido

y es un sin sentido además que una carga burocrática es una carga burocrática para las administraciones por todo ello nuestra enmienda propone directamente ciertas actividades o instalaciones en espacios naturales protegidos aunque sí se deberían permitir actividades tradicionales sostenibles u otras que no puedan colocarse en ningún otro sitio

lo que proponemos es para dos mil cuarenta reducir el cien por ciento de los pinos y eucaliptos en los espacios naturales protegidos y en un setenta por ciento en el resto de los espacios

en la tala sin embargo se ha preferido fomentar una actividad económica que nos parece que es insostenible con pinos y eucaliptos que secan el suelo

y de incendios luego no vale lamentarse si ocurren desgracias

la enmienda número treinta y cuatro es una entre otras muchas enmiendas que hemos presentado debido a la no concreción de fechas

y de aprobación de varios instrumentos de ordenación que se contemplan en la ley por ejemplo una vez iniciado un plan de ordenación de recursos naturales puede quedarse

para no tener que limitar obras como el paso del tav o posibles pozos de gas y ocurre lo mismo con el plan de gestión de especies amenazadas que no hay plazos concretos ni para iniciarlo ni para aprobarlo como por ejemplo el plan de gestión del lobo por ello décimos por esta falta de plazos

nace muerta el gobierno podría declarar el inicio de un plan pero no aprobarlo nunca y se crea una ley

que permite no cumplirla así mismo en la enmienda número cincuenta y tres queríamos poner en contraste las distintas políticas de gestión del suelo que se están llevando a cabo por parte del gobierno vasco en los presupuestos del veintidós por ejemplo hay una partida de cuarenta millónes a sprilur para la compra y adecuación

protegidos y degradados no existe una figura parecida tratar de llegar a acuerdos voluntarios con los titulares

esta misma política de compra de terrenos con fondos públicos por qué no aplicar esta misma política que tienen con el suelo industrial y comprar y adecuar y restaurar los espacios protegidos degradados

akordioak eta arima jarri ditugun partaide guztiok una ley que nace como digo a semejanza de tantas leyes que hemos impulsado los socialistas con la voluntad de acuerdo con el deseo de lograr el más amplio consenso posible en la que todos y todas hemos puesto conocimiento acuerdo y alma quisiera aprovechar la ocasión también para saludar y dar la bienvenida a este pleno a esta sala

su etapa como viceconsejera de medio ambiente asimismo también quisiera saludar a quienes estuvieron trabajando desde el minuto cero en ese proyecto

que también están hoy aquí presentes un proceso legislativo que ha contado desde aquellos primeros pasos previos a la redacción con la participación de la representación de las tres diputaciones asociación de municipios vascos eudel red vasca de municipios hacia la sostenibilidad udalsarea dos mil treinta más de noventa personas de las diferentes administraciones

así como de la sociedad civil anteproyecto en el que se han atendido más de setecientos alegaciones durante el periodo de participación pública durante ya la tramitación parlamentaria se han presentado más de trescientos enmiendas de las que se han admitido o transado más de doscientos de esta manera se ha pretendido elaborar un texto con el mayor grado de cocreación posible entendiendo

patrimonio natural lo es abren escenarios de gran interdependencia

mediante la cooperación y desde luego nunca desde el conflicto o la confrontación ganbera honen gehiengoaren babesa izango duen lege baten aurrean gaude

esta es una ley en la que han encontrado su sitio todas aquellas personas y grupos que han venido con ganas y voluntad de trabajar

en todo lo correspondiente a la protección de nuestro patrimonio natural han pasado veintisiete años desde la aprobación de la ley de conservación de la naturaleza del país vasco de mil novecientos noventa y cuatro tres décadas en las que ha quedado en evidencia el profundo calado que tiene en nuestra cultura la sensibilidad

erdigunera eraman du la ley de mil novecientos noventa y cuatro supone un firme cimiento sobre el que se comenzaron a construir las políticas medioambientales vascas pero es preciso que la actualicemos a las nuevas realidades es preciso que dejemos recogidos los nuevos retos que se nos presentan como sociedad

reflejados los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda dos mil treinta de naciones unidas objetivos relacionados con la salud y el bienestar la educación de calidad agua limpia y saneamiento energía asequible y no contaminante trabajo decente y crecimiento económico

ciudades y comunidades sostenibles acción por el clima

porque el momento presente no solo nos plantea una respuesta meramente legislativa de acuerdo con el informe sobre la evaluación global de la biodiversidad y los ecosistemas del dos mil diecinueve el veinticinco por ciento de las especies de flora y fauna están actualmente amenazadas y un millón de ellas están abocadas a la extinción la mayoría en esta presente década

pero el patrimonio natural no es solo la biodiversidad sino también su continente y así el mismo informe concluye que el setenta y cinco por ciento de la superficie de los continentes

y un ochenta y nueve por ciento de los humedales han sido alterados o han desaparecido razones

a cualquier escala para conservar el patrimonio natural en un momento donde las amenazas a nuestro patrimonio natural parecen multiplicarse

y de políticas que logren frenar el calentamiento global es preciso que este parlamento demuestre tener altura de miras para tomar todas aquellas decisiones que sean necesarias

como que en el último estudio publicado este mismo mes por el gabinete de estudios sociológicos del gobierno vasco sobre las actitudes de la ciudadanía hacia el medio ambiente

al que se sume el treinta y tres por ciento que afirma que ha oído hablar de él pero que no sabe lo que es y es igualmente destacable

ni con el género ni con el territorio ni clase social o nivel de estudios además aunque la pérdida de biodiversidad y espacios naturales es identificada entre los problemas medioambientales

como la contaminación de todo tipo y curiosamente al mismo nivel que la preocupación por el cambio climático y solo el veintinueve por ciento afirma conocer la red natura dos mil la apuesta más importante de la unión europea para conservación de la biodiversidad y a la que euskadi aporta cincuenta y cinco espacios protegidos con una extensión de más de mil quinientos kilómetros cuadrados superando

la media europea del dieciocho por ciento que la gran mayoría de la población desconozca su existencia

quisiera para finalizar hacer un repaso al capítulo de agradecimientos en primer lugar al señor tellería del grupo nacionalistas vascos

que ha demostrado una vez más ser poseedor de reservas inagotable de paciencia y de saber hacer

señora larrea del partido popular ciudadanos agradecerles la voluntad de acuerdo mostrada desde el primer momento por haber sabido anteponer el bien general

por comprender que en los grandes acuerdos nadie pierde y todos ganan

pues bien la defensa del patrimonio natural mediante esta ley que aprobamos hoy y mediante nuestro compromiso personal como sociedad nos debe de doler si es preciso porque

la naturaleza no es un lujo sino una necesidad del espíritu humano tan necesaria como el agua

que estamos mejor en la naturaleza y nuestro pensamiento y sensibilidad esta ley es

los agradecimientos y sin ponerme colorado lo hago con humildad pero sobre todo porque he podido trabajar con la viceconsejera de medio ambiente amaia barredo a la que saludo y también es verdad

me llevaba tengo una gran amistad y creo que ha sido un trabajo

muy bonito que recordaré durante mucho tiempo por la naturalidad con la que hemos trabajado

se debaten nueve es decir se ha hecho un gran esfuerzo también he de reconocer que me da pena no haber llegado a un acuerdo con elkarrekin podemos principalmente porque las enmiendas presentadas básicamente dos no han podido concluir en algo en que todas y todos nos sintiéramos cómodos

perdieron su valor como enmiendas a debatir en ponencia y pasaron a otro escenario

por un lado la creación de la agencia vasca de biodiversidad que exclusivamente dice que asumirá funciones normativas y de gestión de todo lo relacionado con esta ley es decir todo lo que hacen gobierno más diputaciones a partir de ahí solo habla en genérico de que se podrá hacer

y que una ley genere dudas es lo peor que le puede ocurrir a una ley

que no dudo que se produzcan como en tantas otras cosas incluso dentro de nuestros propios grupos parlamentarios pero eso no nos lleva a crear una agencia de grupo parlamentario sino a profundizar internamente para resolver los problemas

al tiempo no son ustedes conscientes de que existen servicios de cuatro instituciones gobierno y tres diputaciones que se aplican en la materia desde hace cuarenta años siguiendo fielmente el reparto competencial que en la materia hizo la lth ustedes creen que

hará desaparecer las descoordinaciones en el debate hemos analizado diferentes soluciones para abordar una mejora de esa coordinación

como hasta ahora defendida por ciudadanos pp hasta la que ha quedado plasmado definitivamente de crear un consejo de coordinación en que participan las cuatro instituciones implicadas

establece que cuando se señale un espacio como susceptible de proteger se deberá hacer una previa ordenación del mismo

mayor o menor con que protegerán las diferentes zonas y la que en consecuencia determinará lo que sí

con estricta protección que zonas necesitadas de menor grado de protección o las propias de la red natura dos mil cuando la propia directiva comunitaria señala que se trata de buscar normas que permitan la convivencia de seres humanos con la naturaleza porque estamos hablando de protección activa

también hay una enmienda en materia forestal en la que había un sorprendente artículo único desmontan toda la política forestal de hace más de ochenta años de este país y crean una nueva con la simplicidad que dicen que en dos mil cuarenta deberá haber

sin ningún rigor científico clasifican de invasoras

se puede decidir una cosa de este calado en una enmienda de un solo artículo de esta ley dónde está el conocimiento científico dónde está eso que ustedes piden tanto de hablar con la sociedad con el sector implicado con los forestalistas o con la ciudadanía y luego está su enmienda con la que prohíben preventivamente

prohibir preventivamente los fitosanitarios y biocidas

se prohíben ni preventivamente ni nada se prohíben pero luego dicen más

si existe amplio consenso científico de ser tóxicos o dañinos qué concepto jurídico es amplio consenso científico no sé dónde

y ya por filosofar un rato de todo este debate de la ley he vuelto a constatar que homo sapiens da lo mismo en sus vertientes desarrollista o proteccionista

en un equilibrio dinámico decidiendo lo que se debe hacer unos suponen la inagotabilidad de la naturaleza otros la necesidad de restaurar equilibrios perdidos decidiendo

algunos les llaman ecocapitalismo y ecosocialismo pero solo es antropocentrismo siempre el hombre como centro de toma de decisión sobre el resto del mundo vivo y aunque alguien no lo vea así sepan que no voy a discutirlo es una constatación es así porque no queda otra decidir proteger la naturaleza y cómo

nadie más lo puede hacer los abordaremos de una manera u otra pero todos actuamos como antropocentristas frente a la naturaleza y aunque esto es irrenunciable

no necesita la felicidad muchas veces hay que dejarla tranquila

no debatir sobre ella de un modo impostor tentación de los llenos de despotismo ilustrado que pretenden desde supuestos teóricos imponer al mundo rural al que tratan de irresponsable el modo de conservar el espacio su espacio vital espacio que por cierto si alguna vez nos fijamos en él para preservarlo

y curiosamente desde antaño siempre estuvo rodeado de gentes rurales

pontifican sobre la naturaleza porque no se puede hacer ya que como dijo

que resulta experimentalmente imposible determinar sus movimientos en definitiva legislar sobre la naturaleza es complejo pero siempre creeré que debe abordarse con la pretensión de buscar el equilibrio entre por un lado la necesidad que el ser humano tiene de reclamar su propio espacio en el medio natural que comparte con millónes de otras especies pero que necesita ser sostenido

su espacio y su tiempo para que se recupere se restaure y se reequilibre como lleva haciendo dinámicamente miles de millónes de años

en su permanente adaptación a todos los cambios previsibles o no y no olvidemos nunca que lo que hay que hacer es protegerla

resulta demasiado esclerótico para lo que continuamente progresa y avanza y termino con una cita de quien considero al menos para mí

el doctor margalef que en su trabajo entre la termodinámica y el juego

pensar que el hombre forma parte de la naturaleza ha de estimular su acción cooperativa con ella pero lo importante es mantener una actitud abierta

en realidad las ideologías más militantes se sitúan un poco al margen de la consideración ecológica porque tienden a ver al hombre como algo muy aparte de la naturaleza

en fin la protección de la naturaleza debe hacerse pensando en ella sin dejar al margen a una especie

aunque sea la especie que más la deteriora esta en el fondo es una ley para protegernos de nuestras propias actividades

porque tenemos un patrimonio único que debemos seguir protegiendo entre todas y todos y esta ley

no servirá si no tomamos conciencia de nuestra responsabilidad nuestra actividad cotidiana tiene un efecto permanente más contundente que el de cualquier otra especie sobre el medio natural

no servirá de mucho si no somos solidarios y conscientes de que este es un trabajo

claro la comisión de coordinación en materia de patrimonio natural es una comisión consultiva primero bien vale pero es que

de medio ambiente y entre sus funciones está precisamente la de promover y apoyar la coordinación entre las distintas administraciones para una mayor protección

ya existe de antes y por cierto también sí me gustaría decirle en este sentido al señor tellería

en la defensa a ultranza de la ley de territorios históricos como muro de contención de la creación de una agencia de biodiversidad que desde nuestra perspectiva podría terminar con esta descoordinación y sin embargo luego a través de la ley de administración ambiental pues bueno nos estamos cargando toda la distribución competencial que afecta a los municipios a través de las pig es sorprendente otra de las medidas enmiendas que parecen hacer a juicio de eh bildu aceptable este proyecto de ley

esto habría que hablarlo si se ha cuantificado de qué ingresos estamos hablando pero en todo caso independientemente de cuánto sean

el problema de la restauración no son los fondos sino que la mayoría

y no son proclives generalmente a permitir proyectos de restauración en sus terrenos entonces ya hemos comentado anteriormente que en los espacios protegidos pues no tenemos un modelo de compra como por ejemplo para el sprilur entonces

a cabo tareas de restauración respecto al impulso de los corredores ecológicos el borrador de la ley ya que presentaba el gobierno

eh bildu ha incorporado ciertos matices también lo hemos hecho nosotras una de nuestras enmiendas sobre los corredores ecológicos

se ha recogido que exige que se permeabilicen las zonas más conflictivas por atropellos frecuentes a la fauna

de que se haya incorporado a la ley esta enmienda

la ley y no desplaza el foco de protección y de interés de la ley de la actividad económica a la protección del medio ambiente que debiera ser como digo el centro principal el objetivo principal de esta ley por lo tanto por todo ello ya digo

nosotros votaremos en contra de esta ley y nos parece que hemos perdido una oportunidad

de reforzar la perspectiva de la protección del medio ambiente a través de esta ley en favor precisamente de lo que tenía que ser

la actividad económica sin control y sin barrera

eta tellería jaunak esaten zuen se puede decir algo de ese calado en una enmienda se puede decir algo de calado en una enmienda pues ya sé que usted no está

la negociación de la ley de administración ambiental pero se pueden decir cosas de ese calado y de mayor calado en una enmienda por lo que estamos viendo o sea que

a las enmiendas y las implicaciones que puede tener porque estamos a punto de hacer saltar por los aires la ordenación territorial de este país a través de una enmienda precisamente besterik

gorrotxategi discúlpeme pero estoy ya muy mayor mire yo estuve

a mí me tocó hacer el borrador de redacción de la ley del noventa y cuatro y ahora estoy

pero lo que siempre se va a encontrar conmigo es un defensor a ultranza estructural en mí de la lth pero no solo porque yo soy un defensor estructural he defendido este aspecto sino porque usted al proponer la agencia vasca de la biodiversidad

explican que había una cuestión concreta de una carretera en álava

servicio de carreteras el de caza y pesca biodiversidad y ura se lían quiénes tendrían que estar en la agencia de

un totum revolutum que no aclara absolutamente nada y en ningún momento lo han concretado esa es la razón y luego cuando habla

de que la comisión de coordinación que se crea que no sirve claro que sirve porque además

si hubieran leído bien el informe de la cojua de esta ley que se refiere a sentencias del tribunal constitucional el medio natural y el medio ambiente son conceptos

a intentar justificarlos y unirlos y no son lo mismo no solo no son lo mismo son absolutamente distintos y por tanto es bueno tener una comisión de coordinación en una materia como es el medio natural

tanto el señor otero como usted señora gorrotxategi no sé qué enmienda

parlamentario estoy involucrado y por tanto la apoyo no tiene nada que ver con una modificación de la lth para nada y desde luego no tiene el calado claro que el calado es algo

cree que el calado para él es importante para mí es mucho más importante el que ustedes intenten cargarse toda la política forestal de golpe en un solo artículo que eso

y ahora vuelvo a usted señora gorrotxategi me ha venido con glasgow

está usted con la producción o está usted con la conservación o la protección y eso es un error es compatibilizar todo lo he dicho en mi discurso

que forma parte de la propia naturaleza es de su biodiversidad y ustedes

en intentar definir qué es la naturaleza y adónde tiene que ir y cuál fue el anterior la naturaleza es absolutamente dinámica y nadie sabe adónde va le he citado la frase de einstein que dice que nadie puede meterse en la naturaleza pero le voy a citar otra de otro

que el nicho ecológico es un hiperespacio abstracto y ustedes

y están intentando concretar lo que es abstracto y eso no se puede hacer es mucho más complejo que todo eso y además nosotros lo que intentamos es compatibilizar crecimiento económico con sostenibilidad medioambiental que es posible porque claro

quiere que le dé la lista de quién fija más carbono de las distintas especies arbóreas que tenemos en este país según un informe del ministerio de transición ecológica la que más el haya

la que menos el haya fijando carbono hablemos de fijar carbono yo no soy un defensor de una especie ni de otra pero la ecología

radicalmente distinta a la que ustedes a veces intentan hacer mire hay un caso lo he dicho alguna vez aquí en el parque de valderejo el mejor bosque de pino silvestre que hay en este país está desapareciendo porque se lo está comiendo el fagus sylvatica el haya y sabe por qué se lo está comiendo porque ha dejado de haber seres humanos

y en el momento que no tienen ganado el haya que es súper invasora se está cargando

gracias señora presidenta buenos días a todos hoy culminamos

en la ponencia para la reactivación de la comarca de ayala en la que hemos asistido a cuarenta comparecencias que nos han permitido conocer a fondo la situación

como ya hemos dicho en otras ocasiones consideramos que lo adecuado sería disponer previamente de un diagnóstico por comarcas de toda euskadi que nos permitiera priorizar el trabajo de estas ponencias

ahora acabamos la de ayala empezamos inmediatamente la de bajo deba y seguimos sin tener claro

y si no estamos dejando atrás a otras comarcas más desfavorecidas pero centrándonos en la ponencia de la comarca de ayala cuyo informe votamos hoy hemos tenido la oportunidad

a las diferentes instituciones involucradas a los agentes económicos sociales a los representantes de los diferentes sectores y a diferentes asociaciones hemos asistido atentamente a la exposición de su punto de vista

y contradicciones y nos hemos empapado de sus sensibilidades y de sus miedos y esperanzas nos hemos encontrado con una comarca

mayoritariamente centrada en el sector de los tubos que debido al proceso de regeneración de renovación energética se encuentra en crisis no solo aquí sino a nivel mundial y que arrastra en su declive

y con ellas también puestos de trabajo y comercios nos hemos encontrado una comarca con un déficit de infraestructuras públicas un poco olvidada y un tanto víctima del efecto centrípeto de las grandes urbes

nos hemos encontrado con una comarca que por estar a caballo entre diferentes provincias tiene necesidad de mayor coordinación de las instituciones

y nos hemos encontrado con una comarca que necesita con urgencia inversiones privadas pero que no las consigue debido desde nuestro punto de vista

por una parte a un elevado coste de la mano de obra

por encima del salario medio y un treinta por ciento más que el resto de competidores en el resto de españa es evidente que este es un factor que aleja a las inversiones por otra parte una alta conflictividad laboral y un elevado absentismo y por tanto una imagen de zona deprimida y conflictiva que disuade

a lo que hay que añadir la falta de personal cualificado y los escasos incentivos

siendo realistas debemos decir que la situación de la comarca desde el punto de vista económico y social es complicada y que su recuperación no es fácil pero para que ello ocurra nos parecen imprescindibles las siguientes medidas que hemos aportado al informe que hoy se vota primera consideramos que es necesario realizar a corto plazo

de los principales agentes sociales y económicos implicados un plan estratégico de la comarca que analice todos los posibles factores de competitividad de la misma

el turismo el sector primario etcétera con el fin de determinar cuáles van a ser los ejes de desarrollo futuro a nivel económico y social y proponer a las instituciones

coherente con lo anterior que tenga como objetivo la reactivación de la comarca en segundo lugar pensamos que hay que crear una mesa de trabajo interinstitucional estable compuesta por todas las instituciones afectadas gobierno vasco diputaciones forales de álava y bizkaia

que tengan como objetivo coordinar los esfuerzos de todas estas instituciones de cara al desarrollo de la comarca

consideramos que es necesario realizar e implementar un plan de fomento del emprendimiento en la comarca capaz de generar una cultura de emprendimiento en los jóvenes

el número de iniciativas empresariales generadoras de empleo y riqueza

un plan de incentivos fiscales de suelo de ayudas económicas etcétera que permita a la comarca ser competitiva

trabajar el asunto de la formación profesional creemos que hay que especializar una de las escuelas que ya existen o crear una si es necesario dedicada a la formación

de alta cualificación capaz de responder a las necesidades de empleo cualificado de las actuales empresas de la comarca y de sus potenciales futuras hemos visto

están bastante bien adecuadas a las necesidades reales y actuales de la comarca de las empresas de la comarca pero tienen o van a tener problemas para dar satisfacción a las necesidades futuras de las nuevas empresas o de los nuevos sectores que puedan surgir necesitamos que la

se convierta en un atractivo para la llegada de nuevas empresas y nuevos sectores

año un plan de imagen de la comarca a nivel de euskadi y a nivel nacional que permita disipar las connotaciones negativas actuales que tiene la comarca

con el objetivo de atraer turismo empresas población e inversiones algunas de estas aportaciones han sido recogidas en el informe otras han sido modificadas para su integración con las aportaciones de otros grupos pero entendemos que el informe final es fruto del esfuerzo de integración que se ha realizado

presidenta señorías la comarca alavesa de ayala y sus municipios llodio amurrio ayala artziniega okendo y los municipios vizcaínos de orduña

han sido protagonistas durante un año de los trabajos de la ponencia de este parlamento para ayudar a su reactivación económica y social ha sido un trabajo amplio con muchas comparecencias

y puntos de vista con muchas aportaciones con perspectivas desde el ámbito institucional económico social sindical rural asociativo técnico y con un trabajo que definiría como por parte de los grupos parlamentarios

con una apuesta decidida para reactivar la comarca mejorar su economía sus infraestructuras y sus oportunidades un trabajo con el que se ha analizado la situación y perspectivas

el medio ambiente las infraestructuras la movilidad sostenible

el desarrollo rural la alimentación agropecuaria un trabajo que ha generado un conjunto de propuestas muchas de ellas inspiradas por las personas comparecientes otras por los grupos parlamentarios con un altísimo grado de consenso que se puede explicar señalando

al primer borrador de conclusiones se pactaron tres de las treinta y siete presentadas por elkarrekin podemos se han pactado nueve

y sí al relato o a la caracterización sobre lo acontecido en los municipios para llegar a la situación actual por bildu se presentaron veintiocho enmiendas y se han pactado veintitrés

de una financiación extraordinaria de veinticuatro millónes de euros para invertir en el menor plazo posible inversión que deberá concretarse en los próximos tres meses a partir de hoy

los veinticuatro millónes se incrementen hasta los veintiséis y que en el plazo de diez meses a partir de hoy las instituciones implicadas realicen un plan estratégico a tres años para dar continuidad a la reactivación económica con financiación a cargo de los diferentes presupuestos con las propuestas de la ponencia se plantea

la recuperación de suelo y edificios industriales que tres millónes vayan destinados al empleo la formación profesional y la cohesión social

destinar cinco millónes de euros para infraestructuras y movilidad sostenible que dos millónes sean para turismo cultura y comercio y que otros dos millónes vayan al desarrollo rural

la ponencia propone la creación de un equipo de trabajo interinstitucional

del desarrollo comarcal y también la relación fluida con las organizaciones económicas sindicales y sociales la ponencia aborda

para mejorar la eficiencia energética y la contribución a la transición ecológica la creación de un centro tecnológico científico y de innovación el respeto al medio ambiente la colaboración público privada desplegar la banda ancha en toda la comarca en empleo formación y cohesión social se plantea la creación de una mesa de inclusión social en cada municipio la atención específica

programas de recualificación en formación profesional crear nuevos grados y la especialización de uno de sus centros como centro de formación de alta cualificación en regeneración urbana vivienda y medio ambiente se señalan actuaciones de regeneración urbana y medioambiental integral

más promoción de vivienda pública vivienda en alquiler y alojamientos dotacionales en infraestructuras y movilidad sostenible

el desarrollo de manera integral del parque lineal del nervión para el ocio y el deporte la instalación de infraestructuras para la movilidad eléctrica de vehículos bicicletas y patines

en turismo y cultura se avanza una oferta integral de recursos y eventos la revitalización de los recursos culturales existentes

interconectar todos los recursos turísticos y culturales

en comercio se plantean actuaciones para potenciar el comercio de proximidad el comercio tradicional así como crear sinergias

en desarrollo del sector rural y de la alimentación agropecuaria se indica la importancia de hacer políticas de relevo generacional de avanzar en la digitalización

la viabilidad del matadero de llodio así como de un centro de transformación para ganado

de una cocina central también y en general para todas las actuaciones y proyectos

la transparencia la colaboración interinstitucional la participación de los agentes implicados así como el refuerzo

de comarca quiero agradecer el trabajo que hemos desarrollado en la ponencia quiero agradecer el alto nivel de entendimiento la colaboración que ha habido

y de la señora zabala porque como decía al principio efectivamente

coral la mejor demostración de ello después de las cuarenta comparecencias y sus aportaciones más los documentos que se nos ha ido entregando es que se presentaron setenta y uno enmiendas por los tres grupos políticos de esas setenta y uno enmiendas aquí llegan ocho de esas ocho

dos de bildu y seis de podemos digamos que están recogidas aunque de forma distinta en los planteamientos que se hacen

las propuestas que se hacen en la ponencia pero los temas relacionados con el comercio con el alquiler con la movilidad por tren con los emprendedores etcétera están recogidas en las propuestas que se hacen de conjunto y yo creo que este dato demuestra que ha habido un trabajo coral que ha habido un trabajo de mucho consenso y que yo creo que debe ser una buena guía y un buen ejemplo de colaboración entre grupos políticos cuando tenemos un objetivo común

isla garbia dela es de resaltar que las transacciones conseguidas

todos y creemos que este es un claro reflejo de la unidad de este grupo de trabajo y de la necesidad de que este informe salga adelante con el mayor consenso posible prozesu osoa

ekonomiko eta instituzionalak kontuan hartu beharko dituzte y deben basarse en seis ejes de actuación reactivación económica y

empleo inclusión social y formación cohesión social y mejora de los servicios públicos

y visión comarcal y estratégica para poder realizar y llevar a cabo estos planes consideramos imprescindible la coordinación entre las distintas instituciones y para ello proponemos

la cuadrilla de ayala y la nueva mancomunidad del nervión

es una de las carencias que hemos observado en las distintas comparecencias y este informe

predecesores este informe esperamos y deseamos que sirva para realmente poder volver a activar socioeconómicamente la comarca de aiara y los municipios vizcaínos colindantes de orduña orozko arakaldo y arrankudiaga

los datos analizados nos demuestran dos realidades para una única comunidad datos que nos dejan a la vista

municipios muy cercanos y la situación cambiante que vivimos mes a mes

y como he dicho anteriormente esperamos que con nuestro trabajo podamos contribuir a la recuperación

y dotarla de mayor estabilidad y un futuro laboral y proyecto de vida para sus gentes queremos hacer llegar a los y las vecinas de esta zona un mensaje sus preocupaciones son las nuestras sus miedos los entendemos

los planes que hoy presentamos y que ahora deberán desarrollar las instituciones implicadas

hay futuro hay opciones de cambio hay posibilidad de revertir la situación y hay estrategia nuestro compromiso era avanzar de la mano cooperar y diseñar herramientas para relanzar la transformación arduraz eta erantzukizunez jokatu dugu

mahaiburu andrea egun on guztioi nuestro posicionamiento ante las conclusiones de la ponencia de aiaraldea ha sido el de la abstención

si bien es cierto que las conclusiones de la ponencia se han recogido muchas de las cuestiones que los ponentes fueron exponiendo para nuestro entender también hay situaciones que se han quedado en el tintero y creemos que se podía haber sido más ambicioso primero hemos sido críticos con el reparto presupuestario nuestra posición era la de adaptar la situación presupuestaria a las necesidades que se dieran tanto en el plan de actuación inmediata como en el plan estratégico atendiendo a las necesidades de los sectores

sin poner desde un principio unas barreras que pudieran limitar acciones futuras también queremos resaltar

que han sido treinta y ocho enmiendas de las cuales se han asumido cuatro y se han conseguido transar otras cuatro sabemos que algunas enmiendas eran valientes

pero bien es cierto que la mayoría de las propuestas que nosotros presentamos eran justas y asumibles y por lo general han sido rechazadas junto a

y es la desigualdad de trato que hay entre la capital de vitoria y los municipios de la comarca desde mi grupo lo hemos llamado vitoriacentrismo y esta ha sido una de las principales causas por la cual hoy nos abstenemos pues

no hacemos una apuesta por la comarca con un cambio de mentalidad y viendo los valores positivos de esta y si seguimos dando preferencia a vitoria frente a otras localizaciones a la hora de realizar las inversiones

no haremos sino agrandar el desequilibrio entre la capital y la comarca esta desigualdad de trato y los problemas administrativos

a nuestro parecer una de las raíces de la desafección de la comarca

como son infraestructuras medios de comunicación o servicios y aunque algunos de estos aspectos sí ya han sido recogidos en las conclusiones y hay propuestas positivas estos otros hay otros como son la desafección de la comarca no ha sido recogida de la forma tan clara como nos hubiera gustado también somos escépticos

nos ha mostrado lo contrario pero también queremos que con este paso que se da hoy aquí y con los planes que se van a desarrollar den prosperidad a aiaraldea y a su gente así como a orduña a orozko a arrankudiaga a arakaldo y también

a los ponentes de la ponencia así como a los parlamentarios y a las parlamentarias que han participado en la comisión pues la verdad es que ha sido con un tono muy constructivo

eguna dela eta hoy día veinticinco de noviembre día internacional de la violencia de género desde el grupo que represento queremos

a las mujeres que estamos con ellas que les apoyamos y que les queremos ayudar

desde el grupo como decía que represento queremos también decirles que a través de este acuerdo reafirmamos queremos reafirmar nuestro compromiso en seguir arbitrando y poniendo en marcha todas aquellas medidas que sean necesarias para erradicar esta

ahal den neurrian bidea elkarrekin decía que primero para conocer un problema es necesario para abordar un problema mejor dicho es necesario conocerlo

de género y en este sentido tenemos que decir que como sociedad hemos avanzado mucho pero sin duda queda camino por recorrer yo quiero destacar algunas cuestiones que me parecen importantes cuando hablamos de la violencia

la sensibilización sobre su existencia que tiene que ir acompañada sin ninguna duda de una visibilización y creo que aquí hemos avanzado bastante tenemos que hablar también de prevención y aquí es importante la educación la educación en valores y este es uno de los puntos

que tenemos en nuestra comunidad autónoma y obviamente no voy a hacer un repaso de todos ellos pero sí me parece importante destacar varias cuestiones la importancia de la detección temprana de las situaciones o posibles situaciones de violencia de género

extensible también al entorno de la víctima de violencia de género porque

personas niños sobre todo que sufren esas situaciones de violencia de género y luego cómo no la atención y la protección

sin duda la coordinación de todos los agentes implicados de todas las instituciones y la formación la formación de nuestros profesionales

bueno hemos recorrido como decía mucho camino desde luego creemos que desde las instituciones han dado pasos importantes

a la vez que los hemos dado en la sociedad pero en la medida en que sigue siendo

algunas fallecen por estas lamentables situaciones y por esta lacra pues creemos que seguir ahondando en medidas que sean necesarias como decía para acabar

a nosotros nos parecía importante que se recogiera en esta transacción yo agradezco a todas las portavoces que han hecho posible este acuerdo creo que todas lo teníamos claro

que apoyamos este acuerdo y yo creo que todas teníamos muy claro que hoy

y creo que es lo importante y lo que va a quedar y lo que va a poder ver el conjunto de la sociedad vasca y como decía nos parece importante y acabo señora presidenta porque le he prometido que iba a ser breve

y también hacer una referencia a las cuestiones que he señalado en mi intervención como son la sensibilización la prevención atención y protección

en el parlamento vasco ya desde el año dos mil nueve muchas veces dos mil seis

relación con estas cuestiones y me parece importante que hagamos una referencia a todos estos acuerdos que muchos están cumplidos pero algunos

en el que desde hace más de dos décadas conmemoramos el día internacional contra la violencia contra las mujeres es un día de apoyo a las mujeres que sufren esa violencia machista sus hijas e hijos sus familiares y amigos

avanzando en el compromiso de erradicar la violencia machista de nuestra sociedad las cifras hablan por sí solas a nivel nacional desde dos mil tres han sido asesinadas mil ciento dieciocho mujeres y cuarenta y cuatro niños y niñas

ha hecho mención a las cifras dentro de nuestra comunidad vasca y además estas cifras aumentan cuando nos referimos a mujeres jóvenes y nos preocupa que el veinte por ciento de los jóvenes niegue la existencia de violencia de género y que además eso haya aumentado

y no podemos olvidar una cosa que detrás de cada cifra existe una vida de una mujer no nos podemos resignar a asumir esas cifras y por eso el partido socialista cumplió a nivel estatal aprobamos en dos mil cuatro la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género siendo una referencia impulsamos el pacto de estado contra la violencia de género para dar una respuesta institucional y de consenso a un problema que consideramos cuestión de estado y además también impulsamos su renovación para mejorar todavía más

ese mayor consenso posible aprobamos el real decreto ley de medidas urgentes

y abordar unos cambios legislativos necesarios para ampliar la protección a las víctimas a sus hijos y a sus hijas

a las administraciones del estado para prevenir y combatir la violencia de género y reconocimos como esenciales los servicios que atienden a las víctimas de violencia de género y además estamos trabajando en este momento en un acuerdo para

la financiación de las políticas públicas que combaten las violencias machistas en comunidades autónomas y ayuntamientos y todas estas medidas han conseguido que españa sea un país pionero en políticas de igualdad y contra la violencia machista

su vigencia el próximo año el partido socialista considera

de conocer el impacto que han tenido el pacto en nuestra sociedad es el momento de evaluar de renovar de actualizar el compromiso contra la violencia de género en el congreso de los diputados volviendo a sumar

en esta materia creemos firmemente que ningún interés partidista está por encima de la lucha de la violencia machista y por eso

avances en defensa de los derechos de las mujeres llevan y han venido llevando nuestra firma hoy debemos también tener que hacer frente a la amenaza de un negacionismo de la violencia de género que se anima desde la extrema derecha

y que pretende la ruptura de estos consensos sociales y políticos

allí donde gobiernan porque no admitir la existencia de violencia específica contra las mujeres es negarla este discurso negacionista de la violencia de género

en nuestra sociedad y rompe ese consenso social y político existente con el que hemos conseguido avanzar en los últimos años

a todo esto el partido socialista reafirma su compromiso con el feminismo y contra la lucha contra la violencia machista

también tiene como prioridad conseguir erradicar la violencia machista en los últimos meses hemos estado trabajando todos los grupos casi todos los grupos parlamentarios en la reforma de la ley de igualdad de mujeres y hombres buscando también de ese amplio consenso en la lucha

esencial esta nueva ley va a incluir importantes mejoras dentro de los cuales se recoge también el refuerzo de recursos humanos económicos

yo creo que el acuerdo que hoy hemos alcanzado es bueno se da en un buen momento que como he dicho es importante hacer esa evaluación para dirigir nuestras políticas públicas en materia de la lucha contra la violencia

machista de la mejor forma posible

a todos los grupos creo que es muy bueno que en estas materias sigamos consiguiendo estos amplios consensos desde luego transmitirle

ella no pudo presentar la enmienda a la totalidad por el accidente que tuvo el día anterior pero hemos trabajado también conjuntamente con independencia de ello para conseguir todos juntos el consenso necesario que queríamos conseguir para seguir avanzando todos juntos

y más de cinco mil mujeres necesitan protección policial de la de la ertzaintza por violencia machista tal como

este año ellas ya no podrán dar testimonio del infierno vivido testimonios como los que estamos escuchando en la campaña diseñada con motivo de este veinticinco de noviembre dando continuidad al trabajo realizado por emakunde el año pasado con mujeres de entre cincuenta y cinco y setenta y nueve años que aportan testimonios reales de la violencia vivida durante muchos años no sé si ustedes habrán podido escuchar estos días

y siempre había algo mal yo estuve cuarenta años aguantando

ahora me toca a vivir testimonios

son los que estamos escuchando reales y emakunde y el departamento y el gobierno vasco nos interpela como sociedad y nos pregunta y tú lo ves porque solo una sociedad atenta detecta la violencia más oculta la más cotidiana y que en muchos casos está normalizada hay compromiso

y durante el día de hoy saldremos a la calle y lo vamos a reivindicar eta erakundeen partetik baita ere konpromisoa dago

que se traducen en facilitarles el camino y acompañarles en los momentos más duros es necesario adaptarse a las nuevas realidades y para eso estamos haciendo esa reflexión

el refuerzo de la coordinación el impulso de la formación de los y las profesionales que atienden a mujeres víctimas y el fomento de la investigación y

de cara a ver cuál es la realidad pues que encajaba perfectamente con lo que estaba trabajando en ese momento el departamento también decía la consejera erronka handia dela

indarkeria errotik kentzeko y que teníamos que seguir trabajando porque nos movía la mejora continua y así es así es coincidíamos en aquel momento

hoy día veinticinco de noviembre celebramos el día internacional para erradicar la violencia contra las mujeres provenga tanto de un hombre como de una mujer es decir

contra las mujeres hoy la fachada del parlamento se ilumina de color lila con su símbolo también en el mismo color y concentración de todos los parlamentarios

ad hoc como emakunde aplaudirán y difundirán la iniciativa y luego qué qué haremos posteriormente para que la situación de estas mujeres mejore y sea digna la sociedad ya no se cree esta defensa en lo que decida de sus postulados progresistas en torno a la mujer tampoco su empeño

en etiquetar al género masculino de violador maltratador agresor o asesino por el simple hecho de haber nacido varón

me han oído verdad desde vox condenamos la violencia que sufren las mujeres de hecho participaremos en el acto institucional que tendrá lugar a las doce en el exterior del parlamento porque somos coherentes con lo que décimos pero la diferencia es que desde vox condenamos toda la violencia sin paliativos la ejerza quien lo ejerza sea hombre mujer menor mayor

origen nacional o posición social en eso nos diferenciamos de ustedes en vox no ponemos el foco en una parte de las víctimas para vox todas las víctimas

sin embargo ustedes lejos de garantizar esa igualdad están promoviendo una guerra de sexos que es ineficaz para acabar con la lacra de la violencia

cada vez más mujeres las sufren no se han preguntado por qué saquemos algunas conclusiones de las partidas presupuestarias cuánto dinero llega realmente a las víctimas

pero sí con satisfacer estómagos agradecidos los maltratadores y asesinos cumplen penas ridículas lo que hace imposible cortar de raíz la situación violenta

en realidad lejos de existir un sistema de protección efectivo tenemos un conjunto de individuos que gastan los recursos que harían posible una protección eficaz de las víctimas

por lo cual es obligación del gobierno vasco y de las administraciones públicas

de todo tipo y en base a ello proporcionar los instrumentos y acciones necesarias tanto para sensibilizar y prevenir cualquier tipo de violencia como para atender y reparar como es el caso que nos ocupa al conjunto de los casos de violencia

desde vox les invitamos a poner en marcha un plan de violencia intrafamiliar sin víctimas de primera y segunda y sin clasificación de victimarios

quiero que mis amigos mis padres mis compañeros cualquiera de ustedes todos tengan acceso a una atención integral y de calidad para poder superar cualquier episodio de maltrato

muy fácil en este parlamento a diario perdón

pero no vamos a entrar en ese juego de debate porque sería un error entrar en él y además quiero decir que como mujer me lo ponen muy fácil cada día en este parlamento en esta tasa democrática pero yo les preguntaría a todos ustedes una cosa muy sencilla ya que estamos en el día de hoy la violencia verbal a la que me someten diariamente en esta cámara es por el mero hecho de ser mujer preguntaría eso la violencia la falta de respeto

así espero que no sea por esto por lo que entiendo que la violencia verbal y las faltas de respeto continuas hacia mi persona